de la situación se la reconozco a la representante de eh bildu pero no es

mínimo interprofesional sea más alto más bajo o medio pensionista es por el nivel de paro que tenemos es por el nivel de paro que tenemos

es por el paro y yo creo que este debate puede ser interesante o no si evidentemente lo situamos en los términos en los que en los países avanzados que tanto se citan aquí pues se sitúa se sitúa voy a referirme primero a las propuestas que hay a la de bildu

tal y como la tienen planteada tiene ya tantos meses y no ha sido tan prioritaria para que la veamos hasta ahora pues que está desfasada y yo creo que

el salario mínimo no sé cuanto no sé si lo que planteaba el psoe hace

previamente se tiene que reunir con los sindicatos y con los empresarios para llegar o intentar llegar a un acuerdo lo segundo que nos propone bildu solo decirles que el gobierno vasco no es hoy competente para subirlo ni bajarlo

poco nada tiene que ver con que se suba el salario mínimo aunque la rgi está referenciada al salario mínimo pero no es el tema ni es el caso

pero ya puestos a ponernos fantásticos y ponernos a hacer demagogia todos pues yo le digo oiga

le emplazo a que ponga el salario mínimo en gipuzkoa pero no sé porqué mil cien no sé porqué no pueden ser mil quinientos no sé porqué no pueden ser dos mil porque yo creo que si hago caso a los sindicatos suizos

por poner un ejemplo o sea no sé porqué con mil cien euros se solucionan los problemas

creo que está claro que no le vamos a votar a favor al señor itxaso pues evidentemente su propuesta queda desfasada porque está hablando del dos mil catorce y ya estamos en el planteamiento del dos mil quince luego me

nunca donde lo pueden plantear que es en el congreso de los diputados y también me sorprende que en su propuesta desaparezca que el gobierno tenga que consultar preceptivamente a sindicatos y a empresarios pero bueno

plantéenlo allí en el congreso y supongo que si es razonable pues habrá un acuerdo para modificar el artículo del estatuto de los trabajadores

podríamos estar perfectamente de acuerdo pero no aporta nada y upyd que decirle rechaza la propuesta del círculo

en el debate insta al gobierno de españa a incrementar el salario mínimo de inserción

cuáles son los países más avanzados de nuestro entorno porque aquí he oído a varios portavoces decir que es que españa tiene un salario

mucho más que suecia que no tiene o mucho más que noruega que no tiene

que no tiene o mucho más que italia que tampoco tiene o que finlandia que tampoco tiene o que islandia que tampoco tiene

cuáles son para ustedes los países más avanzados claro cuando aquí se les oye jueves tras jueves hablarnos de los países nórdicos el modelo el sistema que hay que tener

y hasta donde yo se tienen garantizada una vida digna mejor que la que tenemos aquí con el salario mínimo sea el que sea creo

que teníamos que plantearnos aquí pero que no se lo he oído a nadie

a lo mejor lo que se incentiva es el paro porque hay más gente que se va a la calle

y resulta que tiene menos dinero y se les incentiva más la demanda

pero no sé si lo quieren tener o no lo quieren tener evidentemente nosotros vamos a votar en contra de lo que se ha planteado por todos los grupos

luego si quieren hablamos más de alemania curiosamente los países que no tienen salario de inserción social son los que menos paro tienen

que tiene un doce coma seis por ciento que ya nos gustaría a nosotros tenerlo digo porque creo que ahí estaremos todos de acuerdo en que todos preferiríamos tener hoy

y en el resto de españa y en el reino unido que sí hay pero es para mayores de veintiuno años y en holanda también va por tramos de edad dónde hay como ustedes han dicho muy bien

que también vienen de donde vienen y también todos ellos tienen salario de inserción social pero cuando aquí se habla de los países más avanzados

de verdad estamos hablando de países más avanzados o hemos venido aquí a hacer demagogia con el tema del salario de inserción social

es que ustedes perdonarán pero donde los sueldos son más altos donde menos paro hay es en esos países y a lo mejor están ellos muy equivocados

y nosotros estamos acertados en esta materia y le repito que no se preocupen tanto que el gobierno de españa va a subir el salario

interprofesional ahora bien la pregunta que nos tendríamos que hacer es si realmente lo que decía el señor itxaso

insta al gobierno a la subida inmediata de la renta de garantía de ingresos atendiendo al ipc y a recuperar

supongo que en este caso sí como es competencia del gobierno vasco habrán calculado a cuánto

y si ha de hacerse con carácter retroactivo porque puestos a pedir mire señora arrondo respecto a la modificación de los requisitos para acceder a la rgi introducidos en dos mil once

no se ha conseguido retrotraernos a la situación anterior nos parece injusto que junto a la solicitud de dignificación del salario mínimo interprofesional petición que podemos compartir y compartimos aproveche para solicitar también el incremento de la rgi que no tiene nada que ver un tema con el otro como también le ha dicho

y es injusto porque ustedes pretenden comparar meter en el mismo saco decir que son lo mismo el gobierno vasco y el gobierno de madrid pero por mucho que se empeñen no lo van a conseguir porque son distintos

y ahí están los datos que lo corroboran tasas de desempleo índices de actividad económica cohesión social pobreza a años luz está el estado de euskadi gracias al sistema de protección social que tenemos y que se mantiene a pesar de las dificultades económicas y de las críticas de algunos partidos a las personas que viven en euskadi estar mejor o si se quiere pasarlo menos mal que en el estado respecto al último punto de su iniciativa solicita se den pasos firmes y eficaces para poner en vigor un salario mínimo

en colaboración con agentes sociales y sindicales pasos firmes piden

pasos tan firmes como los que han dado ustedes en madrid donde ni se han molestado en presentar la iniciativa en el congreso de los diputados siendo la cámara competente para instar la modificación que pretenden por otro lado la justificación de su iniciativa dice que según los criterios de la carta social europea el salario mínimo en euskadi

pero se conforman con implantar el salario mínimo interprofesional

por qué en qué basan dicha cantidad cómo ha sido calculada estas preguntas también se las ha hecho el señor damborenea

en el punto primero insta al gobierno de madrid al competente

para que se vaya recuperando gradualmente la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante los últimos tres años no creemos que sea casualidad que lo pida para los últimos tres años y no cinco como la iniciativa original y no mencione los años anteriores cuando gobernando el partido socialista ya perdieron también poder adquisitivo

que ello es debido a que ha transcurrido mucho tiempo desde que se presentó la enmienda hasta su debate por lo tanto creemos que será difícil sino imposible tal y como ya

la puesta en marcha para este año el apartado segundo de la enmienda de totalidad del partido socialista insta la modificación de la normativa estatal

los dos primeros puntos de la enmienda a la totalidad instan al gobierno del estado insisto al competente nos gustaría que lo solicitaran también en el congreso y que cuando vuelvan a tener responsabilidades de gobierno si las tienen y le recuerdo que las han tenido hasta hace tres años de lo que piden y pónganlo en práctica respecto al tercer punto siendo firmes defensores de nuestro sistema de protección social llevamos tiempo diciendo que es necesario

para poder dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca tanto actual como futura por lo tanto será apoyada por nuestro grupo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

coincidimos por lo menos con el señor itxaso en que el problema existe que el salario mínimo interprofesional es insuficiente y que deja en este momento abandonadas a su suerte

a miles y a miles de personas pero a continuación nos dice y nos recuerda la frase mítica de seamos realistas pidamos lo imposible yo creo que hoy más que nunca más que nunca es necesario incluso eso para avanzar ha sido en el pasado y hoy

volver a esas ideas que hicieron posible muchos cambios en aquel momento y que hoy desde la indignación también hay que hacerlos posibles en cualquier caso y luego me referiré a ello nuestra propuesta ni siquiera

es totalmente realista y posible y luego lo comentaré la propuesta que se hace desde el partido socialista proposamen hau beste bide batetik doa madrilek da begirako

nizkioke propuesta desfasada dice

el partido popular desde que está en el poder y que están llevando a esta sociedad también a la comunidad autónoma vasca a una situación mucho peor de la que tenía hace unos años además siguiendo con su argumentación esa costumbre que están

que le dijese al señor maroto que aplique en vitoria gasteiz desde mañana mismo la subida de cincuenta euros a los pensionistas creo que por la misma regla que usted ha manifestado en esta tribuna debería hacerlo ya en la práctica

lo que no es viable es seguir con las políticas actuales el camino de la bajada salarial de la congelación de la disminución de las prestaciones

de alguna manera al igual que el establecimiento progresivo del salario mínimo interprofesional por debajo del umbral de la pobreza que se corresponde además con una realidad salarial y que no corresponde

a costa de que sectores de la población juventud personas desempleadas y pensionistas sean condenadas a perpetuidad a la indigencia

las mismas políticas está realizando el gobierno vasco aquí que en madrid son políticas neoliberales aplicadas a realidades distintas

consecuencias diferentes porque son producto de realidades diferentes también pero son las mismas políticas que están empobreciendo a miles y a miles de personas no entendemos que no se quiera dar ningún pequeño paso en otra dirección

es que el gobierno vasco tome decisiones que mejoren y modifiquen la situación de miles de personas y eso es posible es posible hacerlo y no hay ninguna excusa para que no sea así

yo en los que ha planteado usted señor damborenea no la veo y le voy a decir por qué usted dice que los salarios son bajos por el paro me ha parecido entender

los países nórdicos los países avanzados no tienen salario mínimo interprofesional pero tendrán algunas otras fórmulas correctoras para evitar las desigualdades

desigualdades de esos países lógicamente las diferencias son muy pequeñas comparado con la brecha que se ha abierto en españa

es decir no tienen salario mínimo interprofesional pero tienen otras fórmulas que la cohesión social y que la desigualdad no tenga acto de presencia de esa forma tan notable como está teniendo en españa eso por lo menos

usted dice que subir yo creo que sí lo ha dicho porque al final ha terminado diciendo que subir el salario mínimo interprofesional sube el paro

no tampoco lo ha dicho bueno pues tendré que echar mano del diario de sesiones para ver

los sueldos más altos crean menos paro tampoco lo ha dicho sí lo ha dicho sueldos más altos menos paro

estamos de acuerdo estamos de acuerdo por lo tanto o sea sueldos más altos menos paro luego si el salario mínimo interprofesional tuviera

si usted está a favor de la lucha contra el desempleo y contra el paro tendría que estar por lo tanto a favor de la subida de los salarios esto es lo que yo entiendo pero de su intervención me ha parecido deducir que no era así

por la paz en el mundo se plantea la sostenibilidad del sistema de protección social eso es una cuestión fundamental yo según les tenía escuchado a ustedes creo que también estaban preocupados por ese asunto aunque con otra perspectiva naturalmente sí claro hay que

de protección social hay que buscar su sostenibilidad y tiene que ver con el tema que estamos tratando porque forma parte de políticas de rentas en su conjunto porque

si no tiene empleo claro y por lo tanto de alguna otra manera tiene que cubrirse

a esa persona o para esa unidad convivencial bueno le agradezco al partido nacionalista vasco su apoyo como muestra de agradecimiento le voy a

cuál ha sido digamos porque he dicho en la primera intervención que no solamente es el incremento nominal sino el poder adquisitivo

fecha de incorporación al gobierno por los socialistas en los seis primeros meses era de cuatrocientos sesenta y en los seis meses siguientes se subió a cuatrocientos noventa subió un crecimiento nominal del cinco coma cuatro mientras que el ipc solo fue un tres por lo tanto ganancia del dos coma cuatro y entonces le voy a decir que en el dos mil cinco el crecimiento real fue de cuatro coma cinco en el dos mil seis de uno coma nueve

en el dos mil ocho de uno coma uno en el dos mil nueve de cuatro coma tres

y en el congreso se planteó y además ustedes apoyaron la iniciativa del grupo socialista incrementar cuando se debatió que entonces se hablaba de lo que ahora queda un poco ya fuera del tiempo el incremento del dos coma cinco es verdad que ustedes reprocharon como no puede ser menos en este tipo de

del partido socialista pero ustedes apoyaron

claro la utopía hay que mantener pero conciliándola con otro hecho incontestable la política es el arte de lo posible es decir la utopía hay que mantener hay que mantener el anhelo por

traspasar aquello que parece

pero siempre con los pies en la tierra es decir aquí ya le han planteado otros grupos señora arrondo el planteamiento suyo es coherente con su ideario con sus postulados pero efectivamente

ese planteamiento no tendría acuse de recibo porque no hay competencia en el ámbito del gobierno vasco para establecer

lástima que no tengamos capacidad para establecerlo eskerrik asko itxaso jauna mistoa

proponentes no tiene mucho interés así que tampoco le contestaré señor itxaso cuando le digo el tercer punto es la página en ave maría

insta al gobierno vasco a adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad presente y futura de nuestro sistema de protección social para dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca del siglo veintiuno manteniendo la cohesión social pues vale bien

eso es así y me dice y en esos países nórdicos cómo lo hacen pues oiga pues evidentemente con convenios colectivos sectoriales

porque en todos los sectores en cada país no se gana lo mismo así lo mantienen con convenios colectivos sectoriales no hay ningún gobierno nórdico que fije un salario mínimo para todo el mundo en cada uno de esos países y evidentemente son países donde los sueldos son más altos y hay menos paro

salario mínimo que es lo que le he dicho cuando le he dicho yo que se puede no favorecer la creación de empleo subiendo

estando gobernando ustedes el banco de españa hizo un estudio y el estudio era la probabilidad de salir del empleo para los grupos de trabajadores afectados por las subidas de salario mínimo entre dos mil y dos mil diez y observó el banco de españa

siete puntos porcentuales más que el resto con una subida de cien euros y sobre todo entre los mayores de cuarenta y cinco años

este es un estudio del banco de españa de ese período gobernando ustedes

hoy hemos oído hablar de fedea y de todas esas cosas

consultor de temas laborales de la comisión europea la ocd y la oit que por ejemplo recomienda que para los jóvenes en españa se ponga otro salario mínimo y en alemania

son unos cazurros y no les siguen a ustedes en los planteamientos que hacen

para los jóvenes para los mayores de cuarenta y cinco y para los minijobs cuando alguien

pues a lo mejor deberíamos de plantearnos nosotros algo yo le he dicho que no se preocupe que el gobierno de españa lo

el salario mínimo pero también tengo que decirle que la congelación del salario mínimo

no resta poder adquisitivo la congelación del salario mínimo cuando la inflación es del tres o del cuatro sí y eso lo hicieron gobernando ustedes

qué planteamientos hacemos cada uno y qué es lo que venimos a votar y a plantear

resulta que se hacen unas cosas que cuando ni siquiera los demás las hacemos se nos critica como si hubiéramos roto aquí muchos platos y muchos huevos

el salario mínimo es un medio no es un fin es un medio

para que las relaciones laborales los contratos laborales sean mejores y evidentemente

porque que ganen más dinero unos mientras otros se van al paro a lo mejor a ustedes les parece bien pero a nosotros no nos parece bien y no estamos de acuerdo y mire les voy a poner un ejemplo curioso que es de este año

para que por vía de referéndum se implantara en suiza el salario mínimo y planteaban además de tres mil trescientos euros al mes por eso no me inventé antes cuando les he dicho en la primera intervención lo de los tres mil euros oiga y sabe lo que votaron los suizos

el setenta y seis coma tres por ciento que no que no quería salario mínimo y porqué votaron los suizos eso qué pasa

es una gente claro es que viven tan mal nos tienen tanta envidia

tres mil trescientos euros y votan que no yo lo que les digo

se puede hacer una reflexión si quieran seguimos haciendo demagogia y ya está

propuesta necesaria posible realista nola zelan

a su juicio no se va a conseguir nada para las personas con esta propuesta

a reiterar porque lo han presentado en el lugar equivocado y le están pidiendo que haga deberes a alguien que no tiene ninguna competencia para hacerlo

euroarena que es una cantidad mínima diozu bai baina

que discutimos hoy es un tema que está siendo recurrente con una determinada periodicidad en este parlamento durante esta legislatura porque

somos un país pequeño y por lo tanto necesitamos ser y somos una economía abierta pero si somos una economía abierta en un mundo

necesitamos competir y cada vez más cada vez con más fuerza y con más eficacia y para eso es fundamental

se intensifique no se ralentice como se está haciendo durante esta legislatura necesitamos que

vayan a más en el presupuesto pero también en la eficacia de la utilización de esos medios en la red vasca de ciencia tecnología e innovación y en la evaluación del uso de esos medios generalmente estamos muy satisfechos

es verdad que llevamos muchos años con un marco en el que todos estamos de acuerdo y

un aumento de la inversión que cogió una gran intensidad durante la pasada legislatura donde en el dos mil diez llegamos a la media europea

y en el dos mil doce pasamos con un dos coma doce por ciento generalmente décimos estamos muy bien

está por debajo la media española está por debajo claro o incluso nos comparamos a veces con países lo cual no digo que sea hacer trampa

no indica un afán de conocer realmente la realidad en la que estamos cuando nos comparamos con países nos comparamos con el promedio de regiones

pero si nosotros estamos mirando siempre a los países nórdicos a alemania estamos mirando a un grado de desarrollo

para competir en el mercado internacional tenemos que mirar a las regiones más desarrolladas de europa y como ustedes saben solo dando un repaso stuttgart seis coma cincuenta y cinco por ciento tres veces lo que nosotros tenemos turingia cuatro coma ochenta y uno berlín hiru koma berrogeita hamairu oslo hiru koma hemezortzi

finlandia suecia noruega alemania francia están por encima

por lo tanto estamos mal no tenemos lo suficiente

garantizar que podemos competir adecuadamente no estamos invirtiendo lo suficiente y de la suficiente manera de la manera adecuada para cuando salgamos de esta crisis salir fortalecidos y no con un tejido deteriorado y retrasado

no porque no estamos dedicando los esfuerzos necesarios para hacer eso estamos haciendo

porque lo hemos hecho de planes vacíos de compromisos concretos de financiación concreta no hay un solo plan de los que se han hecho esta legislatura de industria internacionalización reforma de la red vasca no hay un solo plan que tenga

un cuadro de mando con objetivos concretos y financiación para cada uno de los programas una financiación temporalizada en el periodo de vigencia que se prevé para ese plan es un tigre de papel y en esas estamos

que esta legislatura por poner un par de ejemplos las convocatorias que afectan directamente

del dos mil doce al dos mil catorce convocatorias reales han bajado en su conjunto

exactamente un trece coma cincuenta y seis por ciento y el eustat acaba de publicar una nota con los datos estadísticos

un cuatro coma siete por ciento en las empresas un cuatro coma uno de promedio un cuatro coma siete por ciento en las empresas y en esto sí tiene

el gobierno vasco porque destina menos fondos a esas convocatorias y esos fondos tienen un gran efecto multiplicador en fondos privados porque están ligadas a la utilización de fondos privados con esas ayudas con esas subvenciones para hacer

y hay un ejemplo que a mí ya me empieza a doler el ponerlo otra vez en una sesión

hay más pero este es muy relevante y muy representativo de lo que estoy diciendo

lleva toda la legislatura tratando de quitarlo de la circulación

si luego se fuerza un poco dinero saca una cosita pequeña pero se lo ha cargado de hecho y en el presupuesto actual aparece el nombre pero no aparece dotación

sin ninguna descripción que es el que de verdad tiene la dotación y cuando se le ha preguntado en la sesión

para explicar el presupuesto qué pasa con saiotek si va a tener una dotación específica si va mantener las características aún no ha respondido

de este pleno tendrá que llegar y que sea satisfactoria pero saiotek

y para las universidades es un engarce perfecto entre la producción de los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación

a las empresas es un programa tan importante que empresas

que son clientes de los centros tecnológicos para proyectos de envergadura tienen unidades

propias que tienen un gran desarrollo para hacer otro tipo de proyectos porque necesitan dimensiones de proyectos distintas y esto es lo que no se entiende que haya

después de tantos años en los que hemos estado de acuerdo toda una red vasca de ciencia tecnología e innovación con una serie de programas con distintos estratos y actuación distintas dianas todos integrados o todo mejorable pero en un conjunto que tiene sentido y se quita una pieza de ese conjunto

en esa convocatoria huérfanos de otra porque algunos por la dimensión no van a poder

de centros tecnológicos y empresas por ejemplo entonces es algo que este gobierno hace con demasiada frecuencia en algunos departamentos quitar algo quefunciona y no sustituirlo por otra cosa y sobre todo no explicarlo porque si a mí después de tantas veces

de comisión preguntando por saiotek se me hubiera explicado cumplidamente una razón que justifique su desaparición y la aparición de algo que lo sustituye

pero es que no existe aún seguimos esperando

empresas que pueden servir para empresas pequeñas para el acceso al conocimiento tecnológico

como gaitek por ejemplo o etorgai se reducen en la cuarta parte ya sé que hay otros que suben pero no van a la misma diana estamos quitando piezas del sistema sin sustituirlas adecuadamente sin reformular el conjunto por eso nosotros proponemos una transacción que nace

de dos iniciativas en este caso una de eh bildu que le agradezco al señor isasi la disposición plena a construir algo

sin exigencias y la iniciativa del grupo socialista que yo he presentado aquí se habla de otros problemas que tiene la red vasca de ciencia y tecnología e innovación

con los años que llevamos todos los agentes reconocen todas las empresas reconocen que no está resuelto el asunto de la transferencia de conocimiento

hay que hincarle el diente de verdad no con palabras el hecho es que en esta nota del eustat y en un estudio

de una auditoría se dice por ejemplo que este año el dos mil catorce de licencias hay solicitadas ciento treinta y seis en euskadi

deberían de ser unas quinientos y por comparar patentes en dos mil trece en euskadi

en cataluña quinientos cincuenta y seis y no se corresponde con

de la diferencia de ambas economías necesitamos por lo tanto incidir

no con papel sino con medidas concretas que de verdad sirvan y eso tampoco se ve pedimos también que se inste al gobierno vasco a que haga una evaluación eficaz

antes de decidir la subvención que atiende a criterios

a posteriori después de que se haya acabado el trabajo que corresponde a esa subvención y eso es fundamental para ir haciendo una cadena eficaz

para terminar se ha presentado una transacción del grupo nacionalistas vascos y del grupo populares vascos que no puedo compartir fundamentalmente para no extenderme porque ellos lo explicarán

fundamentalmente una la principal no concretan absolutamente nada lo del papel no concretan absolutamente nada hablan de

la reordenación de la red vasca de ciencia y tecnología

contribuyan en mayor medida a la creación de riqueza y bienestar amén ya a ver con qué medidas

dónde está la orientación de esa reordenación de la red vasca de ciencia y tecnología e innovación dónde esta ese nuevo

al que recurren en su iniciativa porque este parlamento no lo conoce no lo conoce las líneas no son el plan y es más con tal desprecio a este parlamento

modificaciones en el plan que está en vigor y aquí no ha llegado es decir hay un plan en vigor se modifica

se basa en esa supuesta modificación que desconocemos toda una transacción a algo que es concreto

no dice nada esta transacción no quiero referirme a pájaros y flores pero es que al final con el pcti si no sabemos como el único argumento

no se puede aceptar porque yo hoy he venido aquí honradamente a proponer algo que

pero a proponer cosas concretas y además basado en hecho como es saiotek en desapariciones que estamos hablando de millónes de euros y que afecta a muchas unidades de empresas importantes y eso

en una transacción que tenga medidas concretas que podamos además al menos en sus referencias conocer respecto a las líneas

de esa modificación del plan de ciencia tecnología e innovaciones que por cierto ha anunciado la consejera que será una modificación a la baja

que sea en esas líneas habla de principios económicos estratégicos pero no tiene una sola cifra no tiene un solo compromiso no cuantifica ninguna inversión y no lo ha hecho esta legislatura en ningún plan

en esta línea una gran parte del crecimiento de la inversión deberá ser protagonizada por el sector privado

también al conjunto de las administraciones públicas implicar a las empresas

objetivo cuantificado no hablo ya del programa no hablo de un cuadro de mando no hay un solo objetivo cuantificado para esa modificación del plan no hablo ya de que estén los ingresos o el calendario no hay ni un solo objetivo cuantificado

para una redacción genérica apoyarla lo siento pero yo he venido aquí

buenos días señorías el partido socialista de euskadi ha presentado una proposición no de ley relativa a las unidades de investigación y desarrollo empresariales que el señor reyes nos acaba de defender su iniciativa va a tener la virtud de aquí hoy en esta cámara

exhibamos nuestra firme apuesta por la ciencia la tecnología la innovación en la convicción de que el futuro de euskadi va indisolublemente ligado a ello si queremos desarrollo económico y competitividad para nuestra tierra y para nuestras empresas

que por lo menos para el grupo popular y otros grupos son claves para el desarrollo económico y la competitividad de euskadi como el tren de alta velocidad también con un horizonte dos mil veinte que no goza de tantos parabienes como la ciencia y la

que hoy nos ocupa el gobierno vasco se encuentra inmerso en un proceso de reordenación de la red vasca de ciencia y tecnología con dos mil veinte

de desarrollo económico y competitividad nos avanzó una primera fase del futuro plan de ciencia tecnología e innovación euskadi dos mil veinte este plan pasará por aumentar del treinta y siete al cuarenta y ocho por ciento el desarrollo tecnológico conseguir un mayor retorno

que el conocimiento se traslade y aplique más a las empresas hacer más rentable el dinero público y entre otros objetivos conseguir algo muy importante sumar una mayor financiación privada esta reordenación aun pendiente de culminar no debería vincularse ni a una menor inversión

sino a optimizar el trabajo que se hace y aplicar el conocimiento que se genera en euskadi estamos hablando de un plan que afectará a la competitividad

a la salud pero también al medio ambiente la agroalimentación la cultura el empleo o los recursos sociales y lo hará para los próximos cinco años

y muy necesario que actualizará las políticas públicas en materia de ciencia tecnología e innovación a la realidad actual en un momento clave para la economía y las empresas vascas

hecha esta introducción resumiendo ni el estado de la cuestión ni el documento de cincuenta páginas en el que se avanza las bases de lo que será el plan dos mil veinte pero sí aprovecho para emplazar al partido nacionalista vasco

y así conocer todos los extremos del plan sus contenidos totales sus detalles su financiación

mientras tanto mientras no se presente el plan mi grupo

como ha hecho el partido socialista de euskadi con su proposición no de ley interferir en el proceso y los trabajos que se están realizando con todos los agentes implicados y menos hacerlo

como los que se alude en su proposición no de ley cuando estos u otros

entiendo y supongo por los resultados de los análisis y evaluaciones realizadas de la política de transferencia de conocimiento realizadas hasta la fecha por ello mi grupo

ni completamente oponerse a su proposición pero tampoco está de acuerdo con la enmienda transaccional que ha llegado con bildu

de echo tampoco creo que ninguno de los grupos de esta cámara defienda con las enmiendas que hemos presentado planteamientos políticos maniqueos que tengan que impedirnos llegar a un acuerdo más amplio del que parece se va a alcanzar hoy

que todavía el gobierno no ha presentado el nuevo plan de reordenación de la red vasca de ciencia tecnología dos mil veinte ante su propuesta señor reyes hemos optado de momento

en consecuencia nos hemos limitado a incidir en dos aspectos de sentido común que de hecho seguro que ya se contemplan en la acción de gobierno y en sus trabajos preliminares que está desarrollando con todos los agentes implicados puede que no queden reflejados expresamente en la fase uno del plan avanzado en primavera pero eso no invalida

nuestro grupo sin más pretensiones pero básicas instábamos al gobierno a evaluar de forma continua y homologada las políticas de transferencia de conocimiento llevadas a cabo

hemos acordado con el partido nacionalista vasco y que en este turno de enmendante que tengo

pues bien la enmienda transaccional en cuestión plantea cinco puntos que paso a comentar rápidamente el parlamento vasco insta al gobierno dentro del plan de ciencia tecnología e innovación dos mil veinte y tras

realizada resultados alcanzados relación con los sectores de actividad y previsible viabilidad

que refleje la realidad de la red productiva y adecuada a la coyuntura actual y en el segundo por que no lo voy a leer íntegro hace referencia a que basándose en la reordenación de la red vasca de ciencia tecnología e innovación impulse el trabajo en red de todos los agentes de ciencia y tecnología incluyendo las unidades

a las que se refiere precisamente su proposición con esa enmienda es posible a juicio del partido popular conciliar la acción del gobierno con la de la oposición no condicionamos de antemano los contenidos del futuro plan ni los programas que decida conservar o cambiar como sí hace su enmienda

y que de los expertos y agentes implicados finalicen sus trabajos digamos que parece más consecuente con la actitud de mi grupo dejar al gobierno

para cumplir sus compromisos y presentar el nuevo plan antes de que finalice el dos mil catorce sin que ello neutralice la acción de control del partido popular

el nuevo plan de reordenación que está pendiente de presentar la enmienda transaccional sin embargo del partido socialista de euskadi y de bildu sin ser ni mucho menos opuesta a lo que yo defiendo constriñe a mi juicio en exceso

como la creatividad y la capacidad de innovación de esta cámara pendiente de que presente

analizar para evaluar evaluar para poner los recursos en el camino de la recuperación económica y sacar lo mejor de este país sacar lo mejor de euskadi estamos debatiendo ahora mismo la proposición no de ley del partido socialista referida al diseño del proyecto de reordenación de la red vasca de ciencia y tecnología dos mil veinte las líneas estratégicas y económicas

líneas estratégicas vuelvo a repetir que sustituirá al actual plan vasco de ciencia tecnología e innovación

fueron presentadas como varios de los que van precedidos en el uso de la palabra han citado fueron presentadas por la consejera el pasado

del propio consejo vasco de ciencia tecnología e innovación y del propio programa también basado en el propio

en estas líneas estratégicas consensuadas con los agentes implicados se establecen unas prioridades en cuanto a las fortalezas que euskadi tiene tanto en la generación de propuestas investigadoras como en la posibilidad que tiene euskadi de productos y de servicios tangibles los diferentes planes han existido hasta ahora ya definían cuáles eran las prioridades o las estrategias que en cada uno de los periodos han tenido que establecer los diferentes gobiernos para generar el impulso necesario de nuestra economía euskadi cuenta con una trayectoria de reconversiones industriales que con mejor o con peor suerte han situado a euskadi con unos índices de credibilidad

muy altos a nivel de europa dicho de otro modo euskadi transmite confianza transmitimos confianza europa

demanda que esos planes industriales tengan un formato específico y las prioridades bien definidas entre otras muchas cosas por supuesto de ahí que se haya sacado adelante el ris tres una metodología de la unión europea de especialización inteligente

puede consultarse también en irekia al igual que el propio documento de líneas estratégicas dos mil veinte al cual he hecho referencia

hay que seguir un determinado formato que también europa nos exige creo que es importante poder remarcar en estos momentos cuáles son los criterios más importantes que a nivel europeo se están evaluando y que en este caso nos están evaluando

para aprovechar todo el potencial científico técnico universidades ya puede haber universidades potentes en cuanto a especialización en investigaciones sobre innovación que

dichos resultados y los convierta en productos o los pueda convertir en servicios de poco habrá valido

que en euskadi sabemos en este caso de lo que estamos hablando también europa

pide tener capacidad científico técnica que sea demostrable y también en este caso euskadi debe de contar con herramientas de apoyo y capacidades de atracción de personas

puede estar haciendo en definitiva euskadi debe contar con capacidades empresariales

avanzadas para ser generadores de empleo y generadores de riqueza innovar con una meta hacer avanzar a nuestro país este es el objetivo de cara al año dos mil veinte europa prescribe especializarse para generar actividad económica es un reto

que debemos de abordar como país europa quiere ser competitiva de nuevo en el mercado global y euskadi siempre ha ido en los vagones de cabeza en este aspecto y también se van a mediar cómo no las capacidades científicas las universidades que sean fuertes en ciertas ramas

qué ramas son las más fuertes qué publicaciones tienen cuántas patentes como consecuencia de la investigación cuestiones en las que debemos mejorar y efectivamente lo vamos a hacer este es el camino definir hacia donde queremos enfocar el país hacia dónde queremos enfocar euskadi en base

en definitiva el camino es el que este gobierno está llevando a cabo primero estableciendo cuáles son las prioridades que nos hemos marcado como país y segundo incorporarlas al plan de ciencia y tecnología dos mil veinte en definitiva

que se vieneelaborando durante todo el año durante todo este año dos mil catorce es a nivel estratégico del que emanan del que van a emanar todas las actuaciones en el ámbito de la ciencia tecnología

en marcha entre estas acciones se encuentra de manera destacada la necesaria reordenación de la red vasca de ciencia tecnología e innovación que ya se ha citado por otros intervinientes también hoy aquí está actualmente dicho decreto

se va a regular y se va a actualizar la composición y el registro de la red vasca de ciencia tecnología e innovación en el cual se van a definir el mapa de los agentes y cuál va a ser su misión y su visión y también en dicho decreto se enmarcan se marcan unos objetivos algunos de ellos incluso también

al año dos mil veinte los programas o instrumentos de financiación se están adecuando según lo que se ha definido en la estrategia o en dicho decreto y es por ello señor reyes no se preocupe que habrá nuevos instrumentos para conseguir los objetivos de excelencia

el plan de ciencia tecnología e innovación que se presentará para su aprobación por parte del consejo vasco de ciencia y tecnología e innovación en próximas fechas

un capítulo sobre diagnóstico y evaluación del anterior plan de ciencia tecnología e innovación dos mil quince y un análisis dafo del sistema vasco de ciencia tecnología

es del análisis de situación mencionado de donde parten las claves de la reordenación de la red

la cercanía al mercado la especialización la excelencia

de relaciones en este caso entre agentes con empresas a nivel de ámbito internacional también por lo tanto para mi grupo lo importante no es la supervivencia de uno u otro programa que permite la financiación de este o aquel proyecto como han querido incidir

que me han precedido en el uso de la palabra y reitero que nuestra máxima vocación es el acuerdo en esta cámara y sobre todo en estos asuntos pero

por la insistencia en la supervivencia de uno de los programas que a día de hoy no existe y que podrá existir de otra forma

y establecidas las nuevas prioridades y las nuevas estrategias una vez de que el plan de ciencia tecnología e innovación dos mil veinte esté aprobado lo importante por lo tanto a día de hoy es tener claros

del plan y ponerlos en marcha dotándolos de los recursos económicos necesarios para que esos programas nos puedan ayudar a conseguir los objetivos definidos

decido finalmente apoyar la transaccional firmada entre el partido nacionalista vasco y el partido popular

a la portavoz del grupo nacionalistas vascos que durante los últimos días ha sido la única que se ha acercado

señora corrales brevemente le agradezco que haya tenido una intervención tratando de ser constructivo porque como le consta en este asunto el grupo socialista

porque no es la primera no es por saiotek yo he dicho en muchas comisiones

que los planes que está haciendo este gobierno concretamente

son papel y nada más que papel porque no tiene compromisos no tiene objetivos cuantificados con los indicadores correspondientes porque no planifica sobre todo en cada programa la temporalización

no se puede negar hay muchos planes pero no hay contenido y fíjese me dice que

y yo le he dicho en mi intervención que puede ocurrir saiotek

pero lo que no se puede hacer nunca es algo que es necesario y que está funcionando como una pieza más de un conjunto que es lo que he dicho antes eso eliminarlo y no sustituirlo por nada eso es lo que no se puede hacer

porque hay otros planes claro pero todos esos agentes no pueden acudir a algunas de las convocatorias se podía explicar con tiempo pero

por lo tanto quita saiotek que no sé todavía por qué que son muchos millónes y sin embargo reclaman que hay que aprovechar a las universidades cómo

si se quita saiotek que es el instrumento cómo dígamelo usted pero cómo de verdad porque yo hago propuestas concretas y me contesta con un discurso muy general que

y ya está pero no hay nada concreto además dice hay que definir a donde queremos enfocar el país pasado el ecuador de la legislatura y

en el dos mil trece dice que costará años recuperar lo perdido y en unos indicadores diferencia con el nivel máximo previo a la crisis

menos baja un once coma ocho por ciento en el paro registrado record de parados ciento dieciocho más que al inicio de la crisis

esto es lo que estamos no un ejercicio teórico

en el que estamos discutiendo académicamente sobre las bondades de un modelo que nos van a presentar unos consultores que no que no que no que ustedes tienen que gobernar hoy

pero dedicarse anticipar el futuro sin compromisos en lo que presentan y no solucionar los problemas de hoy estropearlos como saiotek eso no es ser eficaz

dejar sin algún comentario a la señora ruiz la verdad es que a mí sinceramente su intervención me ha dado la sensación de que ha querido disimular que es oposición yo no sé si eso sirve para otras cosas pero usted oposición aquí no ha hecho

pero yo no sé si lo que ha dicho usted lo aquilata bien lo que está claro es que ha hecho el papel que

aquel que sostiene a un gobierno pero usted creo que su oposición o era no sé en fin dice usted una firme apuesta por la ciencia tecnología y la innovación hay otros temas como el tav oiga que

el tren de alta velocidad pero aun así una firme apuesta y cómo es eso si resulta que el gobierno de españa

porque ha sido tan brutal el corte que ha sido a golpes a hachazos y azadas en toda la investigación española que todos los expertos

el gobierno del partido popular cuando deje el gobierno de españa pero qué apuesta

cuando diga algo piénselo porque es que es mentira ahí le digo es mentira

está indignada con la actuación del partido popular en investigación

y dice usted que nosotros interferimos en el proceso de análisis del gobierno claro

el sector se queja de algo yo vengo aquí y pregunto que es mi labor controlar al gobierno la mía que soy oposición la suya no sé interferir claro que quiero interferir

para modificar en el sentido que políticamente yo creo relevante se debe actuar

señor reyes decía steve jobs que cuando se innova se corre el riesgo de cometer errores

y continuar con otra innovación está claro que nada ni nadie es infalible

que aún no ha presentado el gobierno y que el partido popular prefiere darle margen temporal antes de prejuzgar su contenido como ha hecho

y aquí estaremos la oposición usted y nosotros y otros más para denunciar y el gobierno para rectificar

con mi enmienda transaccional no se equivoque no se blinda

y no se impide el control por parte de la oposición pero una cosa le digo señor reyes lo decía einstein si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo

resulta que es usted un conservador y que el escollo para poder llegar a un acuerdo es conservar unos programas que ha habido hasta ahora

además en su intervención en su justificación a la proposición no de ley

tiene que hacer que conservar tiene que darle carácter estructural y simultáneamente si fuera posible si fuera necesario

indicaran es fácil de combinar ambas cosas

preferido ser más prudentes yo entiendo que es una tentación para un parlamentario como usted que ante mi escasa experiencia parlamentaria

y me diga que disimulo ser oposición mire otra cosa no pero llevo

algo sé si yo hoy he querido tener una postura que no sintoniza con la suya no significa que yo no sepa hacer oposición significa que hago una oposición

oportuna para mi grupo político creo sinceramente que

evaluación de políticas públicas a expertos vascos nacionales e internacionales

intergubernamentales de coordinación entre las políticas de euskadi de españa de la unión europea lo menos que puede hacer la oposición o así lo ve mi grupo es

tiempo tendremos para decir si le falta concreción si le faltan contenidos o si no compartimos el total de ese plan

en mi primera intervención he optado por no resumir ni reproducir el documento que avanza las líneas estratégicas y básicas del plan de ciencia tecnología e innovación

la postura de mi grupo lo haría diciendo que comparto los objetivos del plan del avance que

todos los diagnósticos que se han hecho sobre el sistema vasco de ciencia tecnología e innovación también destacaría la coordinación

en la que se va a enmarcar con españa en la unión europea y especialmente el concepto de gobernanza

en áreas seleccionadas donde podamos construir una ventaja competitiva sostenible a partir de ahí insisto mi grupo ha preferido no precipitarse y ser más paciente eso es no hacer oposición porque usted lo diga

a ver la enmienda que no dice nada hombre no dice nada

en serio por lo menos la literatura y la redacción que no concrete no concreta más porque le estamos diciendo que preferimos esperar a ver lo que concreta el propio gobierno con su plan

pero esperemos que cuando este se presente vamos a llegar a acuerdos y sintonizar más

el plan actual señor reyes llega hasta finales de este año dos mil quince el plan actual ha tenido y por el momento tiene herramientas

la elaboración del borrador que aún no se ha terminado del nuevo plan con

dos mil veinte se está evaluando el plan aún en vigor el nuevo plan tendrá nuevas herramientas financieras como las ha tenido el actual plan por lo tanto

que no le van a faltar ni concreciones ni herramientas financieras al igual que no le han faltado al actual plan este gobierno el departamento de desarrollo económico señor reyes claro que reconoce la relevancia

empresariales porque como centros de investigación que son debemos de identificarlos en un mapa de la red vasca de ciencia tecnología

que a otros agentes de la red vasca de ciencia y tecnología este gobierno el departamento de desarrollo económico tratará de mantener

e innovación y efectivamente las unidades

de la red coincidimos con usted y con todos los grupos que han intervenido en que deben de ser

nuevos instrumentos y se harán modificaciones a los ya existentes que observen la ayuda a una gran realidad como son

lo que son las prioridades del plan que ya han salido prioridades y líneas estratégicas que ya están consensuadas en el consejo vasco de ciencia y tecnología y que la consejera

de este mismo año recordarles lo que son los objetivos del plan vasco de ciencia y tecnología

en ninguno de ellos como líneas estratégicas hemos podido ver que se habla de la posible pervivencia de las herramientas de financiación como objetivo

porque son herramientas absolutamente necesarias las herramientas financieras sí

pero no dejan de ser una consecuencia del plan por lo tanto reordenemos la red

aprobemos un nuevo plan y establezcamos unas nuevas herramientas financieras debemos de incrementar la eficiencia debemos de continuar con la senda de crecimiento

europa pero adaptando los programas y los instrumentos tenemos mucho retorno pero queremos mejorarlo ese es el objetivo porque hay nuevas empresas que han podido acceder a los programas desde otros ámbitos y se quiere verificar los retornos también cómo no eta bukatzeko hay un dicho en ingles que es

hoberena debemos ayudar a las empresas el gobierno

y debe ayudar a las universidades a completar sus capacidades a conseguir que den su mejor versión el gobierno debe de ayudar siempre

de las propias empresas que son las que deben generar más economía más empleo y prosperidad porque euskadi necesita a sus empresas eskerrik asko